hemos abordado una problemática existente sobre todo en las instituciones más pequeñas se trata de posibilitar la cobertura temporal de los puestos de secretaria intervención

de que a día de hoy un gran número de puestos reservados a este personal están vacantes o sin que la persona titular esté ocupando el puesto esto deriva principalmente de las jubilaciones que se están produciendo en los últimos años a esto hay que sumarle la complejidad que supone para una pequeña entidad

a los que no están habituados y que no forman parte de su día a día se trata de puestos clave y que desempeñan funciones públicas necesarias por un lado la de secretaría

y el asesoramiento legal preceptivo y por otro lado el control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria así como la contabilidad

hace que en numerosas ocasiones haya que acudir a la figura del nombramiento con carácter temporal lanpostu horiek bete gabe egoteak

eta zuk badakizu señor urkullu si tiene que tomar medidas impopulares yo no puedo tomarlas por usted

como se lo dije en su momento y usted lo sabe esta semana ley un tuit

dos mil veintiuno un informe de la universidad de gotemburgo que leyendo las cuarenta páginas pues

a la lectura que se hace del mismo se trata una vez más de un ejercicio de propaganda a la desesperada begira gauza bat esan nahi dizut aurreko

y en dieciséis largos meses la actitud de este gobierno ha sido la de eludir responsabilidades porque cuando pedíamos más test

cuando decíamos que había que acelerar las vacunaciones nos dijeron que

esta semana un día que estado de alarma sí y otro día que he estado de alarma no y al día siguiente todo lo contrario y no hay quien se aclare

izan geroztik medidas impopulares son medidas impopulares

ha tenido que aplicar y usted dice que está dispuesta a compartir las medidas impopulares me lo dice a mí se lo puede decir a todos los sectores que viven de su égida se lo puede decir por favor desgobernua atzoko

herenegun ezagututako azterketaren emaitza irakurriko dut país vasco es la comunidad con el mejor servicio sanitario del estado según el informe de la federación

la pandemia es global y las soluciones son globales es cierto que no tenemos capacidad de compra de vacunas tampoco el estado y asumimos la compra centralizada de la unión europea

es cierto que nos conducimos en parte por una ley orgánica de salud y un estado de alarma que le recuerdo ustedes también aprobaron su prórroga también es cierto que nuestra capacidad de autogobierno

rgi superior al ingreso mínimo vital refuerzo de profesionales de salud o educación

creo que hoy vamos a hablar de buenas expectativas hacia el futuro caminamos con paso firme hacia el fin de la pandemia la vacunación

ayudan a ver ya un horizonte de recuperación en relación a como estábamos antes del inicio de esta pandemia el sector del turismo es uno de los sectores más castigados más afectados por esta pandemia con él se ha trabajado con intensidad durante todo este tiempo el gobierno vasco ha invertido

reflotarlo y de ayudarle en este tiempo tan difícil pero en estos momentos pasamos de la política en cierto modo pasiva a la posibilidad de la política activa para entender lo que significa el sector del turismo en euskadi el último año de referencia fue el dos mil diecinueve

estábamos creciendo casi al cuatro por ciento con respecto al año anterior y

una porción importantísima para la economía y para el empleo

recuperar esa situación y poder mejorarla es posible yo creo que hace unas semanas hace un par de meses

verano se nos echaba encima demasiado rápido quizás en estos momentos podemos empezar

de una forma mucho más esperanzadora y por eso la feria de fitur una internacional de turismo de las dos más importantes que hay en el mundo la próxima semana abre las puertas después de haber cancelado el año anterior y después de haber retrasado la de este año

muchas novedades y se va a ver también el potencial que tiene

para la economía y para el empleo euskadi siempre ha sido un puntal de esa feria siempre ha llevado allí sus novedades y atractivos con los que queremos recepcionar el turismo de todos los lugares en este país incluso con el que queremos que el turismo interno también se mueva y por eso la próxima semana es una fecha muy importante para la promoción económica y para la promoción turística de este país y por eso

sede parlamentaria justo unos días antes de la celebración de este importante acto y es que

usted nos pueda contar aquí qué lleva a fitur qué va a exponer ante los ojos de todo el turismo de españa

europeo y mundial para que euskadi sea uno de los destinos atractivos que

empezar a caminar con paso firme a partir de la superación de esta pandemia que nos ha llevado hasta esta situación gracias

efectivamente fitur es uno de los grandes referentes para el sector turístico

y euskadi efectivamente ha acudido habitualmente a esta feria para mostrar su oferta turística las novedades en materia de turismo exponer los recursos y productos de los diferentes territorios y municipios que lo solicitan

y es que se trata de la primera gran feria turística que se celebra presencialmente en este dos mil veintiuno

y seguirá sirviendo de escaparate de la oferta turística de euskadi al mundo este año dos mil veintiuno

y con unas condiciones muy diferentes a las de otras ediciones debido a las restricciones de aforo

y a la situación del sector turístico precisamente en este contexto desde el departamento de turismo comercio y consumo consideramos más necesario que nunca acudir a esta feria por los siguientes motivos en primer lugar como decía al principio el sector del turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia

del setenta por ciento en dos mil veinte y muchas empresas sin poder ejercer la actividad en un año

a las agencias de viaje que han tenido que hacer frente a las devoluciones de reservas

por ello como bien ha mencionado pusimos en marcha el plan de sostenimiento del turismo y las

están recibiendo ya los importes correspondientes a esos dieciocho millónes de ayudas y además hemos convocado ya

que lleva el departamento ayudas que este año hemos querido adelantar y agilizar y que están dotadas con otros tres millónes de euros se trata de apoyar

con ayudas al emprendimiento a los proyectos territoriales turísticos y a la creación y promoción

en segundo lugar la presencia de euskadi en fitur es importante porque la promoción del destino no debe detenerse incluso en una situación de limitaciones de movilidad internacional se trata de adecuar la promoción para mantener la imagen de euskadi presente como destino seguro variado y de calidad

mantenga el destino permanente en la memoria ante la siguiente fase de recuperación y en tercer lugar el sector

donde poder acompañarles y reforzar su presencia impulsando sus contactos estimulando la dinamización y facilitando la actividad de los profesionales y empresas por ello

que el papel protagonista sea de las empresas y de los profesionales del sector turístico queremos además que este protagonismo sea compartido también con los territorios que nos acompañan a través de diputaciones ayuntamientos comarcas y asociaciones

y sus recursos por todo ello la presencia de euskadi en fitur en este dos mil veintiuno va a pivotar sobre el eje del trabajo de

de las empresas que han estado resistiendo volcadas en innovar reinventarse y trabajar en la recuperación y es que euskadi cuenta con un sector competitivo formado y preparado para afrontar el futuro y vamos a estar en todo momento a su lado

alta en euskadi se podía haber pedido el estado de alarma

que no es verdad que últimamente han dejado la puerta entreabierta en esta decisión

encima de la mesa actuales cómo valora el gobierno y el lehendakari le pregunto la actual situación sanitaria eskerrik asko

contratar más personal ampliar camas qué uso se va a hacer en este caso de la necesidad de los recursos de la sanidad privada

el reto en realidad es no tener que llegar a paralizar

pero nos encontramos con un problema que es un poquito parecido también y es que la semana pasada nos anunciaron que piden supimos que piden voluntarios para la vacunación en araba

los voluntarios se piden para hacer una mudanza para acompañar a hacer algún recadito o

no parece que sea algo muy serio aste honetan bertan izan da

konkretuak eskatzen ditu apueste por el refuerzo de la sanidad pública

exclusivamente con debates sobre estado de alarma sí estado de alarma no centrémonos en lo que es importante que es el pulmón de nuestra comunidad y que es tener una sanidad de calidad para situaciones difíciles con un personal que no esté agotado tenemos una oportunidad ahora con la ley antipandemia que no sea una ley que se dedique a regular el castigo que sea una ley que se dedique

estamos en buena línea casos positivos por debajo del cinco por ciento

el índice de reproductividad lleva dieciséis días por debajo de uno esto anticipa el descenso de casos positivos la vacunación avanza

interterritorial ha planteado de ante la ingente cantidad de vacunas que parece que van a llegar

los sanitarios jubilados puedan participar en la administración de la vacuna en todo caso el sistema sanitario público ha ofrecido siempre respuestas y no ha necesitado derivar pacientes a hospitales privados la programación de operaciones no urgentes se podrá retomar pronto si se mantiene el descenso de las uci al ritmo que he mencionado

y la confianza la no modificación de la ley orgánica de salud en su momento los autos del tribunal superior de justicia

a la que tanto he apelado han limitado nuestra capacidad pero ya está

no nos vamos a detener en lamentaciones tenemos un decreto en vigor con medidas y recomendaciones muy claras la proposición de ley señora

la disposición que hemos manifestado a recibir las aportaciones las hemos recibido todavía este martes las de su grupo parlamentario en todo caso

reducir al mínimo la tasa de incidencia e incrementar al máximo la vacunación con las vacunas de las que dispongamos ambos objetivos tienen una meta compartida

con ello alejar la situación de tensión asistencial en hospitales y uci

nos corresponde comenzando por cada uno de nosotros y nosotras limitar la movilidad y las agrupaciones mantener la distancia interpersonal y la burbuja social todo

las tasas de incidencia acumulada en siete y catorce días para conseguir reducir el número de personas fallecidas así como la ocupación de camas

jaun andreok hoy ya no hablamos de futuribles ni de hipótesis el pasado día nueve finalizó el estado de alarma y la responsabilidad del presidente del gobierno y de quienes respaldan se ha consumado

la carencia de un marco jurídico adecuado supuso el pronunciamiento contrario de los jueces al mantenimiento del toque de queda a los cierres perimetrales parece en fin

aunque con muchos dientes de sierra en algunos indicadores como usted sabe

de riesgo minoritarias es verdad en nuestras calles su socio el señor sánchez afirma todos los días que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos de sobra para actuar frente a la pandemia

a diario paradojas con un denominador común que

nada indica que esta situación lehendakari pueda cambiar en breve y por ello le pregunto cómo valora usted la situación en euskadi en relación a la covid diecinueve

con esperanza pero al mismo tiempo con una autoexigencia

y una esperanza fundada en función de los datos que ahora estamos trabajando pero en tensión

yo creo que en ese contexto hay paradojas y broncas de usted y se lo explicaré paradoja de paradojas es que por ejemplo la señora delegada del gobierno de su socio el señor sánchez en madrid

y sin embargo cuando usted pide lo mismo o muy parecido para euskadi del señor sánchez no accede a la solicitud le ningunea y además se permite darle

no pensaba hacer nada le ha dejado inmóvil clavado en el sitio y ya es tarde para reaccionar

y yo mismo y solo queda poner trapos en las vías de agua abiertas en la lucha contra la pandemia

hace quince días usted hizo aquí alarde de la unidad de su ejecutivo lo recordará entonces la señora mendia pedía estado de alarma a la carta usted aquí mismo en la puerta de la cámara lo rechazaba sin embargo según el señor erkoreka no lo descartan

de esa manera al menos digan lo mismo todos ustedes

pronto sigue echando broncas hace cuarenta y ocho horas cuarenta y ocho exigía a los ciudadanos menos individualismo menos egoísmo más solidaridad

pero ni un ápice de autocrítica hoy le hemos escuchado aquí al revés hacer autobombo

de gotemburgo que por cierto que se den una vueltita por aquí que vean lo que dice la gente la gente está

está hasta aquí mucha parte de esa sociedad por la mala organización de la vacunación

la primera enfermera murió aquí en el país vasco gipuzkoa era la peor provincia de toda europa

la hostelería está en pie de guerra por sus restricciones mire yo voy a ser claro por supuesto que la pandemia pone a prueba a toda una sociedad

y ante el espejo a los gobiernos a su gobierno también y no basta con echar la culpa a los demás

como hace su socio el señor sánchez son los gobiernos los que tienen que tomar decisiones las normas normas acordes a la legalidad por cierto
sabemos lo que ha hecho eskerrik asko iturgaiz jauna denbora agortu zaizu

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz con respecto al plan jurídico le invito a que usted

hemos venido haciendo en relación a lo que era también las opciones alternativas a lo que era un estado de alarma y dónde ha estado el partido popular en todo este tiempo

el nueve de mayo yo no conozco en el congreso de los diputados que se haya tramitado tampoco su proposición de ley señor iturgaiz en todo caso vayamos a lo sustancial la tasa de incidencia acumulada ha fluctuado en diferentes tiempos pero de manera similar en euskadi y en todas las comunidades en euskadi lo hemos vivido

hoy estamos en trescientos cincuenta casos son quinientos menos vivimos otro periodo en febrero hoy son trescientos menos que entonces el descenso del periodo actual comenzó el veintiséis de abril los incrementos

por lo tanto insisto en lo importante responsabilidad y compromiso individual y colectivo

las medidas cuentan con toda experiencia y garantías la vacunación avanza la tensión hospitalaria y de uci está bajando estos catorce meses hemos hecho un gran esfuerzo

aun sin contar con medidas eficaces que lo eran al amparo del estado de alarma he escuchado hasta ahora sobre la dureza de las medidas en euskadi como también lo contrario

coincidencia también en lo emocional en cuanto a los resultados señor iturgaiz los datos objetivos son claros en euskadi más test y más vacunas que la media del estado menos personas enfermas y menos personas fallecidas esto no ha terminado ni mucho menos tenemos que seguir combatiendo

desde el verano en euskadi cada ola ha tocado techo con una tasa menor le pido que sea usted porque aun pudiendo hacerlo yo no quiero hacerlo le pido que sea usted quien haga el ejercicio de identificar la relación de comunidades que en algún momento han estado en los mil o más casos

en euskadi en noviembre ochocientos cincuenta enero seiscientos cincuenta

en mayo estamos en trescientos cincuenta y bajando esto significa que las medidas adoptadas la labor de osakidetza y el esfuerzo realizado por la sociedad vasca

los datos demuestran el valor de este esfuerzo compartido mire señor iturgaiz además todas las instituciones vascas hemos aportado ayudas directas líneas de crédito avales reducción de tasas e impuestos ayudas fiscales aplazamientos de pagos bonos de consumo

usted ha venido insistiendo también en el pasado en la hostelería

estas ayudas están entre las más altas del estado y el resultado es positivo educación presencial por encima del noventa y ocho por ciento actividad cultural y deportiva abierta y cumpliendo los protocolos actividad económica industrial y comercial abierta eskerrik asko

actuaciones y oculta otras y yo creo que tiene una gran dificultad para ver cuál es la realidad y por eso no le gusta que nosotros hagamos una función de control que tal vez usted no quiera o no pueda hacer

adoptar una actitud que es la de mentir a este parlamento usted vino hace dos semanas al pleno de control diciendo en torno a una actuación concreta de la empresa

ni antes ni durante ni después ningún tipo de contacto

unas horas después estos matones estos mafiosos dan imágenes efectivamente poniéndole a usted en entredicho y desautorizándole totalmente dejándolo en evidencia lamentablemente señor erkoreka tiene más credibilidad hoy

que un vicelehendakari y eso me parece lamentable demostrando realmente que la verdadera patraña es la que usted contó en este parlamento

y posiciones ultraderechistas este era un ertzaina de los que actuaron en esta manifestación contra ernai de la forma más violenta

esa asociación que usted dice que es perfectamente legal y que le digo yo igual de legal

este tipo de simbologías y que exaltarían a este tipo de grupos pues este ertzaina de uniforme

etb sino de uniforme y de servicio está exhibiendo este tipo de actuaciones gazteak langileak ostalariak

mire usted está empeñado en elevar a categoría de

individuales que son susceptibles de responsabilidad y depuración de sus conductas por mecanismos que usted como jurista conoce perfectamente y sabe que se tramitan a través del ejercicio de control que ejerce sobre este parlamento con respecto a la foto que me ha enseñado compruébela si es real o no y si se corresponde a ese día o no porque ese día el traje de la ertzaintza era diferente llevaban manga larga o sea que compruebe

y le está haciendo una campaña a la empresa a través de los medios de comunicación esta misma semana han puesto en circulación un vídeo virtual

que para lo único que ha servido es para que esa empresa sea conocida ahora por mucha más gente posibles demandantes de sus servicios por cierto mire

colectiva de animadversión con respecto a ningún colectivo ninguna ya le he dicho además que las actitudes

con esas que usted de violencia extrema que usted ha recogido sin embargo sí hay actitudes colectivas

que lindan con el odio como estas por ejemplo que explicitan

de odio contra la ertzaintza fíjese lo que dice denok gorroto dugu polizia

que están en las puertas del delito de odio del artículo quinientos diez del código penal mírenlas porque estas sí que están organizadas estas sí que son colectivas y auspiciadas por ustedes y estas sí que pueden estar en el origen de un delito de odio gravísimo

depuraciones y actuaciones personales que se pueden perfectamente tramitar resolver

disciplinarios para aquellos que con fundamento con bases probadas y acreditadas pueden demostrar que efectivamente se han producido actuaciones

un año del acuerdo firmado por el gobierno de madrid y euskal herria bildu donde expresamente se acuerda derogar la reforma laboral y señora mendia también le queremos interpelar por el cumplimiento de este acuerdo ya que su partido también es firmante del mismo como han dicho los sindicatos

tiempo de cumplir con este acuerdo y tiempo de cumplir también con los compromisos del programa de su gobierno en madrid

esta necesidad de cumplir con lo acordado porque la reforma laboral impuesta por el gobierno del pp no ha hecho no hace más que acrecentar la injusticia la precariedad y la exclusión y ello porque esta reforma laboral como conviene recordar supuso la rebaja de las indemnizaciones por despido poner alfombra roja a los ere que algunas empresas

quieren aprovechar para ello reinventaron las causas a las que las empresas pueden acogerse para justificar los despidos colectivos la reforma laboral inventó reinventó un concepto de crisis

no solo en base a pérdidas actuales de la empresa sino también en la posibilidad de tenerlas ampliaron el concepto de crisis no solo a las dificultades económicas y o productivas de la empresa sino al hecho de disminuir los beneficios y ahí está un ere para destruir empleo presentado

eliminaron el control de los ere por parte de las consejerías de empleo de los gobiernos autonómicos

hoy la última palabra en un ere la tiene la empresa en su caso queda por cuenta de los y las trabajadoras corregir los abusos de las empresas en un control judicial dificultoso y a posteriori como ha ocurrido con el ere de la empresa pcb del grupo itp una sentencia declaró la nulidad de noventa despidos despidos que no debieran haber ocurrido nunca

sindicales de tubacex en huelga indefinida desde el once

nos hicieron llegar la necesidad de derogar esta parte perniciosa de la reforma laboral de la que también están siendo víctimas la reforma laboral condiciona la acción sindical y la negociación colectiva como instrumento básico en la mejora de las condiciones laborales

a los convenios colectivos vencidos por el fin de la ultraactividad centraliza la negociación colectiva

y estatales lo que ha supuesto en nuestro ámbito un deterioro de las condiciones laborales la negociación colectiva como fuente de creación de normas de forma acordada en el marco jurídico actual se incluye en un modelo de regulación de relaciones laborales en las que el estado tiene competencia exclusiva

por lo tanto cuando en la reforma laboral se incluyen medidas dirigidas a la estatalización de los convenios y por tanto también de los ámbitos de negociación supone perder uno de los pocos instrumentos que en nuestra comunidad tenemos para regular las condiciones laborales por ello creo que abogar por la derogación de la centralización de la negociación colectiva operada por la reforma laboral

probablemente se me vaya a contestar que el ámbito competencial para la derogación de la reforma laboral no está aquí pero las reglas de juego impuestas por la reforma laboral si están aquí

que desde su gobierno pueda poner en marcha por muy ambiciosa que pretenda ser y por eso también lo planteamos en este parlamento porque cuando hablamos de cómo defender el empleo

estas políticas de empleo no existiera o no importara handiak dira mendia andrea aurrean ditugun erronkak enpleguari begira

al mismo partido de quien preside el gobierno de españa y quien tiene el compromiso desde que asumió la responsabilidad política de dirigir ese partido y cuando llegó al gobierno

pero yo en este parlamento comparezco como miembro del gobierno vasco y como responsable política en euskadi y por lo tanto si me permite señora garcia voy a dar respuesta desde esas responsabilidades que estamos haciendo

a muchas de las cuestiones que se demandan por parte de los sindicatos en una festividad tan señalada como la del primero de mayo y vamos a responder además

intervención vinculadas a la reforma laboral

no están en la agenda de este gobierno y entre las que usted cita no está algo tan novedoso como lo que sí estamos haciendo y lo que estamos haciendo

a preguntas del grupo socialista y les expliqué

de que desde el gobierno vasco estamos diseñando una estrategia vasca de empleo que queremos compartir con el parlamento que mira al año dos mil treinta y que quiere generar un nuevo derecho

en algo tan importante como es la formación permanente para el empleo garantizar su empleabilidad de manera permanente para que no pierdan ese empleo es decir llegar antes de que se genere el problema por lo tanto

va a ser fundamental para atajar esa precariedad que ambas compartimos como una preocupación el derecho a la formación y a la activación para el empleo

muy ambicioso y que forma parte de esa estrategia que le señalo muy trabajada con los agentes sociales y económicos y que es un pacto además que compromete también al gobierno vasco y también compromete como le decía como es una estrategia que mira al año dos mil treinta compromete también no solo a este gobierno sino también a los próximos gobiernos

otras dos legislaturas más por lo tanto yo he pedido comparecer en este parlamento y además he pedido comparecer de una manera especial que sea con propuestas de resolución porque me parece que es importante escuchar a todos pero no solo escuchar sino que todos

de aportar y enriquecer esa estrategia porque tiene que ser la hoja de ruta que nos marque el empleo que queremos en el año dos mil treinta y ahí

esa estrategia vasca de empleo que todos podamos compartirla y que todos podamos trabajarla cada uno desde dónde estemos desde nuestras responsabilidades eskerrik asko

egun on berriro desde el inicio de la pandemia sabemos que vivimos tiempos de incertidumbre aún mayores para el empleo para lo que va a ser más necesario que nunca políticas que antepongan las personas frente al mercado laboral

esto exige una política de empleo integral esto es no solo políticas con capacidad para activar la búsqueda de empleo que son importantes entre ellas la formación para el empleo es cierto pero también es necesario proteger y acompañar cuando no se accede al empleo y a esto se llama también disponer de las políticas pasivas de empleo

y no le he oído en su intervención tampoco echarlas en falta o reclamarlas he leído la estrategia vasca de empleo dos mil treinta que ha aludido presentada por su gobierno y le voy a decir que resulta difícil hacerse una idea cómo se puede salir de la inercia hasta ahora de las políticas de empleo sin contar con nuevos instrumentos resulta difícil

liderazgos y valentías para plantear el debate del empleo en su integridad sin corsés creemos que hay que abandonar la perspectiva mantenida durante años y que como hemos visto no da los resultados que necesitamos la perspectiva para

limitarse a hacer lo que se pueda con los escasos instrumentos y competencias que tenemos la perspectiva para elaborar la política pública de empleo debe basarse en el debate para saber qué necesita la sociedad vasca para que en estos tiempos de incertidumbre

se pueda garantizar un empleo de calidad y se pueda dar a la gente la protección social suficiente si lo pierde o no accede al empleo

y los resultados están ahí un panorama laboral caracterizado por el desempleo y la precariedad usted dice que se limita a hablar como consejera de empleo del gobierno vasco y deja el tema de la reforma laboral

pero creo que los sindicatos vascos cuando han salido a la calle también interpelan a este gobierno y también piden a este gobierno

porque yo creo que las trabajadoras que se han manifestado en este primero de mayo y los sindicatos saben que es incompatible presentar estrategias para un empleo de calidad y mantener en vigor una reforma laboral cuyo objetivo es precisamente lo contrario pero cuando solicitamos

hay que derogar la reforma laboral para repensar un nuevo modelo de relaciones laborales espainiako lan ministroak

señora garcia a ver le resulta difícil ver cómo se puede hacer algo por el empleo en euskadi sin contar con nuevas herramientas bueno yo creo que en euskadi desde el gobierno vasco y este parlamento ha sido testigo del impulso que se ha ido dando a lo largo de todos los años de autogobierno desde que se aprobó el estatuto de gernika de cómo los vascos

extendiendo derechos con nuestras herramientas propias y le voy a poner un ejemplo reciente

pero hemos construido la renta de garantía de ingresos también lo hemos hecho con las herramientas a nuestro alcance por lo tanto yo siempre he tenido confianza en las instituciones vascas y en el autogobierno vasco y en la capacidad de que a través del acuerdo y el trabajo constante podemos mejorar la vida de la gente

y creo también en el compromiso existente por parte del gobierno de españa en el congreso de los diputados para modificar y derogar esa reforma que yo coincido con usted no tiene que ser una derogación sino

de este siglo a la altura de lo que nos demandan las circunstancias que estamos ya intuyendo que vienen en este nuevo mundo de las relaciones laborales en el siglo veintiuno

yo me voy a centrar como le decía en mi primera intervención en lo que considero que podemos hacer y que estamos haciendo desde el gobierno vasco y creo que su grupo puede aportar mucho en este debate que tendremos en las próximas semanas y tiene que ver con todo lo que forme parte de las competencias del gobierno vasco

ni tampoco en un nuevo marco de relaciones laborales vasco pero sí que está expresamente la lucha contra la precariedad recogida en esa estrategia y expresamente

y creo además poco o más novedoso puede haber que la extensión de derechos para los trabajadores y por eso en euskadi queremos dar

los retos que nos vienen en el futuro y no poner parches y constituir nuevos derechos para la ciudadanía vasca

atrás y eso también está recogido en el programa de este gobierno vasco para esta legislatura compartimos la necesidad de impulsar un empleo de calidad inclusivo

porque de cada una de esas definiciones pueden desgranarse un montón de acciones de políticas públicas en beneficio de las trabajadoras y de los trabajadores no coincidimos en el planteamiento que algún sindicato hizo en ese primero de mayo respecto a la huelga general porque eso

puede servir como desahogo como derecho es verdad está ahí pero como salida en estos momentos creo que aporta poco lo que

esta nueva estrategia que pretende buscar un pacto para que gobierne quien gobierne en los próximos diez años tengamos un rumbo fijo en el campo y esto obviamente nos apela a quienes estamos en el gobierno pero también a todos los que están en los escaños de esta cámara y también a los agentes sociales que tienen

colectiva creo que es el mejor instrumento que ha habido en la historia

citaba usted como referencia este primero de mayo yo pertenezco a la organización política que celebró el primer primero de mayo hace ciento treinta y uno años en las calles vascas por eso sé bien cómo se han ido mejorando las condiciones de trabajo y a la vez la productividad de nuestras empresas por eso porque lo sé bien y creo que es como mejor hemos progresado apelo de nuevo a la negociación y al acuerdo para afrontar

y llamo a los agentes sociales a que utilicen la oportunidad que tienen en la mesa de diálogo social aquí en euskadi para buscar esos consensos ese diálogo y esos acuerdos necesarios para seguir avanzando en beneficio de las trabajadoras y de los trabajadores eskerrik asko

filial de repsol como usted sabe una de las

con millónes de euros de beneficios actuales viene poniendo en marcha y planteando una serie de medidas lesivas para los derechos de las y los trabajadores en su planta aquí

en bizkaia en los últimos tiempos entre esas medidas algunas de facto ya están suponiendo la destrucción de empleo

el expediente de regulación temporal de empleo que ya está puesto en marcha un expediente de regulación temporal impuesto por la empresa sin acuerdo sindical producto

por buscar la precarización futura de las condiciones de trabajo y que ha sido impuesto a pesar de que las y los trabajadores objetan para que no haya habido un acuerdo

en la empresa estamos por lo tanto en nuestra opinión ante de nuevo una gran empresa con importantes beneficios a la que le da igual pasar por encima de todo

incluso por encima de los propios acuerdos que la empresa firmó con los trabajadores

hace apenas un año nosotros pensamos que los gobiernos tienen una obligación

a la hora de proteger las condiciones de trabajo sino también a la hora de respaldar a las y los trabajadores ante decisiones que nos parecen absolutamente abusivas por eso

como usted bien conoce tiene las puertas abiertas a trabajadores y empresas vascas y el contacto permanente con todas y absolutamente todas las empresas en conflicto y este departamento como el ministerio de trabajo se ofrece a la mediación en los términos que prevé la ley que usted bien conoce esto es

implicadas así lo pidan al gobierno de momento no hemos recibido ninguna propuesta por parte de ninguno y lo que nos queda es confiar

en este caso puede ser la mejor salida a la situación por la que pasa esta empresa en concreto que usted hoy nos trae al parlamento o cualquier otra y

al real decreto que regula precisamente estos procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos

finalizado sin acuerdo y con cambios en cuanto a la fecha de efectos y la intensidad en la suspensión de los contratos en ese tiempo la inspección de trabajo realizó el informe correspondiente y además hemos hecho como siempre

para llegar a un acuerdo sobre la mejor solución para afrontar las dificultades por las que está pasando la empresa a falta de propuestas en este sentido nosotros como le comentaba a su compañera apostamos por la negociación colectiva como la mejor herramienta para solucionar y llegar a acuerdos

y sus trabajadores su representación de los trabajadores gracias

señora mendia apelar a la negociación colectiva está muy bien lo hacemos todas las fuerzas

lo hacemos pero desde luego en este caso como en muchos otros creemos que al gobierno hay que pedirle algo más que apelar a la negociación colectiva por una razón muy concreta es que la empresa está incumpliendo unos acuerdos producto de negociación colectiva de hace apenas un año y sobre el incumplimiento de esos acuerdos que destruyen empleo

cuestiones en materia de formación que además implican al departamento a la propia lanbide que de alguna manera está implicada en la formación que estaba pactada por la empresa y los trabajadores y que la empresa ha incumplido está incumpliendo y que va a dejar en la calle a las personas que han formado parte

lanbide por lo tanto la negociación

es evidente que en este caso no ha habido buena fe por parte de la empresa y a veces hay que posicionarse de un lado o de otro no para que las cosas sean blanco y negro sino porque a veces es necesario porque una de las partes no actúa de buena fe y lo estamos viendo en multitud de grandes empresas y petronor

hoy a este parlamento la traen las trabajadoras y los trabajadores que se manifiestan ahí fuera o su comité está aquí

que actuemos con más eficacia y que nos pongamos de parte de los trabajadores cuando las empresas abusan para mí es fácil los trabajadores me han traído

lo que necesitan las y los trabajadores en este tipo de actuaciones es que los gobiernos con las y los trabajadores porque de nuevo es un abuso empresas con miles de millónes de euros de beneficio lo que están planteando es una estrategia para precarizar el empleo para destruir puestos de trabajo porque quieren pasar por encima de todo porque lo único que les importa son sus beneficios millónarios en una empresa además con unas puertas giratorias con el mundo de la política en euskadi espectacular y por lo tanto el gobierno pueda ir mucho más allá

mendia andrea zurea da hitza señor hernández usted precisamente conoce perfectamente

las relaciones laborales y sabe perfectamente lo que se puede y lo que no se puede hacer y estamos haciendo de verdad le digo lo mismo que el ministerio de trabajo

lo mismo ahora bien si usted me plantea qué es lo que hace este departamento además de lo que ya he dicho hoy

como así se lo he señalado también a la señora garcía que estamos desarrollando desplegando la estrategia vasca y por lo tanto yo creo que con posterioridad además usted conoce el propio ministerio de trabajo ha aprobado también una estrategia de empleo alineada

y conoce también el foro de la mesa de diálogo social donde se está abordando cómo reforzar la protección de los trabajadores que es el foro donde debe de hacerse

formamos a las personas trabajadoras en empresas en crisis y lo hacemos también acordamos políticas públicas relacionadas con la formación de los trabajadores con la igualdad en las empresas en fin que la apuesta debe de ser

utilizar las herramientas a nuestro alcance y una de ellas es la mesa de diálogo social

la negociación colectiva que como señalaba es la mejor herramienta para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras vascos gracias eskerrik asko

inportantea da es muy importante entender y comprender que tiene que ser así porque

que el mal funcionamiento o la inoperancia de la comisión año y medio estuvo sin funcionamiento sin consultas en un año donde ha habido un cambio de gobierno

nombramientos de personal del gobierno sin memorias de los últimos años más preocupante o grave que esa inoperancia o inactividad o mal funcionamiento

hasta la fecha dictámenes que se dedican a construir tesis exculpatorias para no reconocer el mal proceder de la mayoría de las consultas denuncias o quejas

hori ez da etikoa entonces la diferencia entre lo legal y lo ético

bilatu zituen puertas giratorias de libro y no es porque lo diga euskal herria bildu sino las instancias internacionales entre ellas una de las más referentes transparency international en su definición de libro eta

por cinco personas de las cuales tres directamente sois miembros del gobierno y cargos de confianza muy lejos de los estándares europeos para este tipo de órganos de fiscalización o

nació cuatro días antes de la inauguración del instituto de la memoria gogora cuatro días antes y en pocos meses recibió adjudicaciones de allí y de varias instituciones locales para la organización

de gogora recayó directamente en estali cuatro días antes de empezar en concreto el instituto de la memoria un organismo dependiente en aquel entonces de lehendakaritza a día de hoy no contrató en veintiocho ocasiones al grupo montai conformado

del partido cargo público y candidato y en las que trabajan también otros cargos activos del partido y las adjudicaciones no estamos hablando de peccata minuta ascienden a setecientos sesenta y dos mil euros pasados

una consulta sobre este tema edo deian ikusi dezakegu consulta sobre las contrataciones de gogora el instituto de la memoria pide a la comisión ética que analice veintiocho adjudicaciones del grupo

whatsapp bitartez cómo se hacen consultas informales a la comisión ética señora garamendi

eta hau da aurkezpen karta esta es la carta de presentación en estos momentos de la comisión ética del gobierno vasco en base al código ético y de buenas prácticas una comisión exculpatoria una comisión de cuartadas una comisión meramente estética año y medio sin funcionar sin consultas

memorias de los últimos años dictámenes que se dedican a construir tesis exculpatorias eta horregatik horregatik garamendi andrea galdetzen dizugu ea

trataré de hacerle ver que esa afirmación no tiene base aun a riesgo de no lograrlo

es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio comienza haciendo referencia al asunto en que

una vez abandonaron el gobierno comenzaron a prestar servicio en la empresa privada este asunto ya fue objeto de una pregunta parlamentaria

además como bien saben esta cuestión ya fue dictaminado por la comisión de ética pública

como asunto uno barra dos mil veintiuno en dicho dictamen y más específicamente en sus apartados trece a dieciséis se recogen de manera muy clara

se recuerda que existe un procedimiento de compatibilidad que todo cargo público debe seguir para poder desarrollar un trabajo en la empresa privada que se extiende hasta dos años tras el cese de la responsabilidad pública todo ello encuentra su base señor estarrona en la ley uno barra dos mil catorce

es una ley aprobada por este parlamento a la que nos conduce a que la comisión de ética pública tenga un ámbito concreto y que las compatibilidades tengan otra vía diferente ley de este parlamento que usted obvia totalmente a la hora de realizar sus reflexiones como si no estuviera

la objetividad y la rigurosidad de la comisión de la labor de la comisión son incuestionables

de que lo que se dictamina no es la voluntad exclusiva de esta consejera de este gobierno sino fruto de un análisis exhaustivo

con la buena praxis en la gestión de lo público así es señor estarrona dos miembros del gobierno y dos externos reconocidos expertos

como puede verse por lo tanto un órgano colegiado y paritario

menciona la ausencia de memorias en los últimos años y aquí sí debo de darle la razón

ha habido un retraso no obstante no quiero extenderme en excusas y ya le anuncio que dichas memorias se encuentran prácticamente finalizadas y que tras su traducción y maquetación serán convenientemente publicadas

y todas sus cargos públicos en los últimos años por ejemplo a través del ivap

por las que ha pasado un elenco de autoridades en la materia en dichas jornadas se han tratado temas de gran relevancia como el reto de un buen gobierno y el derecho a una buena administración o la integridad institucional para cargos públicos personal directivo y funcionariado este gobierno forma a quienes ocupan cargos públicos e implementando los valores principios y comportamientos recogidos en el pionero código ético y de conducta que firmamos y compartimos los y las cargos públicos

fue recibido por el lehendakari el año pasado sin ir más lejos e impartió una ponencia en torno a la integridad del sector público la quinta evaluación de este grupo sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en gobiernos centrales y fuerzas y cuerpos de seguridad sitúa a euskadi como modelo

el informe mencionaba tanto el código ético y de conducta como la comisión de ética pública los calificaba como especialmente innovadores en el momento en el que se pusieron en marcha y añadía que se trata de una buena práctica que podría servir de inspiración el propio índice europeo de calidad de gobierno

para medir la calidad de los gobiernos regionales esta misma semana además revela que en euskadi la buena gobernanza es una práctica arraigada en nuestra labor diaria este estudio ha confirmado a euskadi a la cabeza de las comunidades del estado español centrándonos en indicadores como la calidad de servicio público o la baja corrupción

clave del buen gobierno la propia regulación del código ético y de conducta ya prevé además mecanismos de control estrictos para las y los cargos públicos en el caso de que quede acreditada

la contravención o el cumplimiento insuficiente de las normas éticas y de conducta previstas en el código ético

de delito o infracción administrativa no se trata de lo que usted ahora políticamente le conviene que sea la comisión de ética pública se trata de hacer un trabajo riguroso que garantice la integridad y la ejemplaridad pero también sujeto a normas claras y precisas

por qué no para ofrecer un marco claro a nuestros cargos públicos para poder desarrollar de la mejor manera

de servicio público para eso estamos aquí como ve señor estarrona todo ello me lleva a insistir en la defensa férrea de un sistema ejemplar y que funciona se puede mejorar probablemente todo tiene un margen de mejora

si ese es realmente su objetivo poniendo en duda la labor de un órgano paritario y colegiado con personas expertas e independientes de una trayectoria incuestionable

eskerrik asko me alegra la celeridad que algunas o las capacidades que tenéis de leeros los informes de manera tan rápida y pormenorizada me ha negado usted la mayor a la hora de decirme que la comisión ética

yo le voy a negar también la mayor lo del órgano paritario es que casualmente ahora se ha tenido que renovar por la renovación del gobierno pero casualmente y esto son casualidades

uno de ellos no fue no persona cercana al partido sino es que fue cabeza de lista

un respeto absoluto a su persona pero de los dos independientes en ese órgano paritario cabeza de lista en unas elecciones entonces pues bueno si nos hacemos trampas al solitario nos hacemos y usted alude a instancias europeas y los informes y lo que han dicho sobre la comisión de ética y el código ético y buen gobierno etcétera claro en base a lo que ustedes nos cuentan

conjuntamente con ellos y les planteamos las cosas que hay porque en este país en este país y en este gobierno exactamente así como órganos fiscalizadores y auditores hay tres uno el tribunal vasco de cuentas públicas con el señor bilbao a la cabeza

lo que sabe lo que sabe tenemos la oficina de control económico

ha sido miembro del araba buru batzar nada más y nada menos ese señor

que es usted parte parte del gobierno también y como digo pues

mucho mucho que desear pero un poco aterrizando otra vez no son prejuicios

cuatro años retraso inoperancia absoluta eso ya no es un retraso cuatro años sin memorias y el secretario ahí sin voz y sin voto de acuerdo cuántas veces ha sometido a votación algún dictamen de los sesenta y nueve cuántas

la mesa al menos otro asunto que dirimir y que ayer mismo los grupos que sostienen al gobierno intentaron esconder bajo la alfombra haciendo uso de su mayoría parlamentaria pero se quedaron solos ante el resto de la oposición zeren eta gobernu batek asmatu dezake

ya sabemos y como le he dicho en la primera intervención en qué dirección va a ir también el dictamen de la comisión ética en cuanto a las inoculaciones irregulares y vacunaciones

porque es la de exculpar cualquier tipo de responsabilidad se van a dedicar otra vez a maquillar

de dudosa ética como lo han hecho hasta la fecha e incluso ante las evidencias públicas evidencias públicas porque están los hechos

no ni durante ni antes ni después hubo relación y luego al día siguiente se ve claramente en un vídeo que sí que hubo y que también en sede parlamentaria el señor erkoreka

y no decir la verdad o no reconocer las cosas no es una actitud ni correcta ni ética y no tener una actitud proactiva para que no se den este tipo de actitudes

betetzen ditugu zalantza izpirik gabe entonces en dos mil catorce

que suscitaron un amplísimo nivel de consenso del que la formación a la que pertenece fue partícipe

sino que la propia portavoz de su grupo político en aquel entonces la señora mintegi

como se ha visto que cuando se comparten los objetivos es posible llegar a un gran nivel de acuerdo planteábamos una cultura de diálogo y de respeto hacia los demás lo cual se ha integrado en el texto

altísimo nivel de acuerdo y objetivos compartidos respeto hacia los demás qué ha cambiado señor estarrona

lo único que ha cambiado parecer ser es su percepción particular ez dituzu

erabakietan creo firmemente en el servicio público y en este sentido desde la responsabilidad que me corresponde como presidenta de la comisión de ética

en la que se recoge en buena medida su espíritu dice la finalidad de la ley es así la satisfacción de un deber ético por quien ejerce esas funciones públicas

pues trata de preservar la legítima confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el interés común así como la transparencia de su actuación en la vida política esta cuestión debería estar por encima de la confrontación política no puede convertirse en un arma arrojadiza

estamos hablando de un suelo ético ampliamente respaldado por esta cámara un suelo firme

no se trata solo del presente se trata de garantía de futuro de una forma de hacer política

que queremos dejar sólidamente asentada a las próximas generaciones nos jugamos mucho no juguemos con ello esan duzue ekarpenak egingo dituzuela

carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren

muchas gracias presidenta buenos días consejeras señorías bien en la víspera de

de agricultura fundamentalmente de política agrícola

iniciativas y hemos presentado esas iniciativas por el interés de una cuestión muy importante que es fundamental para la economía española también para la economía vasca que es la futura pac la política agraria común y su renovación las respuestas en noviembre pues eran bastante preocupantes

de lo que es la posición vasca o las negociaciones en relación con la nueva pac

en concreto la pac post dos mil veinte su gestión y su desarrollo

de este gobierno y también a políticas de los territorios históricos por sus competencias en agricultura que son muy relevantes como todos ustedes saben y yo en ese sentido lo que quisiera en esta interpelación es información de la señora tapia

la discusión o para un debate es para conocer la posición vasca la de su departamento y también si en la medida de lo posible la de las diputaciones forales porque ya que no son parte

las tendrá que representar y en ese sentido supongo que usted como mi grupo apuesta por una

la autonomía alimentaria y que fundamentalmente también ayude a esos nuevos retos de estabilidad de modernización

de estabilidad de nuestros agricultores y productores y los nuevos retos en relación con la biodiversidad con el medio ambiente con la cadena alimentaria que se ponen sobre la mesa es muy interesante también en todo este devenir seguir las publicaciones de organizaciones profesionales vascas entre ellas

el interés de ese sector y la dependencia por lo que puede ocurrir ver con la importancia de esta pac

futura la importancia como un instrumento esencial en la política económica europea y en su dimensión ciudadana regional y su desarrollo social rural alimentario etcétera ese es el elemento básico y clave no por eso es tan importante que también

un momento en esas circunstancias porque va a ser una cuestión esencial no solamente hablando de los fondos que vendrán sino de cómo organizar una nueva política

definitivamente en marcha que previsiblemente será en dos mil veintitrés pero

que nos afecta en este momento dos mil veintiuno ha sido un año por decirlo así después

en marcha de lo importante primer semestre con la aprobación de los reglamentos de la futura pac en ellos se estará se está el segundo semestre con los ajustes de españa del ministerio

dentro de un momento porque así lo dice el ministerio y dos mil veintidós aprobación para su aplicación en dos mil veintitrés o sea ahora lo importante

a finales de este año es decir y cuando vamos al documento del ministerio

de noviembre de finales de noviembre del año pasado vemos en su punto cinco que es

en el que se preserve el papel de las comunidades autónomas en el segundo pilar vemos un elemento también de reflexión habla tres veces de las comunidades autónomas en una primera cuando habla que el plan estratégico que tiene que redactar el ministerio es un nuevo instrumento propuesto por la comisión para aplicar la pac en cada país

con el reparto constitucional de competencias de nuestro país y de las comunidades autónomas en el caso de las comunidades autónomas son muchas las competencias en relación con esas cuestiones y en la nuestra de una manera mucho más singular

un papel clave en las comunidades autónomas tanto en lo que se refiere

como esencialmente en las intervenciones del segundo pilar quiero decir que la consolidación de los dos pilares de la pac son el primer pilar que financie las ayudas directas y las medidas de mercado íntegramente con cargo al fondo europeo agrícola de garantía el feaga y el segundo pilar en favor del fondo rural en

dos pilares importantes donde las comunidades autónomas aparentemente dice que tienen algo que decir pero luego en la práctica parece que solamente se habla del segundo pilar bueno usted nos podrá definir porque usted está en la negociación esto es más teoría lo que diciendo el plan estratégico también dice en la segunda fase en la que habla de las comunidades autónomas debe ser una oportunidad para mejorar las sinergias entre

es decir y ser diseñadas por las comunidades autónomas pues son las mejores conocedoras de la realidad y de las necesidades de sus territorios eso lo dice también o sea que eso tiene que formar parte del plan estratégico

debe incorporar a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión es decir ustedes al tiempo que tiene que asegurar la necesaria coordinación a nivel nacional dice muchas más cosas en relación con la subsidiariedad etcétera etcétera pero bueno yo he dicho lo básico el papel además

en algo que es esencial y que va a ser esencial para nuestro futuro o sea que es una nueva pac

sin duda los trabajadores y las condiciones laborales ya hemos visto también cómo hay una mayor preocupación además en relación con esas condiciones de los trabajadores del campo la biodiversidad

pero también en principio menos presupuesto es decir más obligaciones y menos

previa hasta que la definición sea la que vaya a ser pero en este momento hay que pensar que hay que hacer más con menos

que nos preocupa desde luego a mi grupo parlamentario

estas cuestiones hacen que estemos preocupados también por el plan estratégico español en relación con esa dimensión y esa negociación con las comunidades autónomas como algo esencial por eso el tiempo pasa muy deprisa además en la confección de esta nueva pac

las tres instituciones comunitarias consejo parlamento y comisión dieron el pasado marzo un impulso definitivo a la negociación

con vistas a un acuerdo a junio después de lo que ya se decidió en octubre

diferentes para el veintitrés de abril desde que se iniciaron las conversaciones

y por eso nuestra posición y nuestra inquietud es saber cómo a la vista además de que el gobierno de españa prepara ese plan estratégico para la pac en colaboración con las comunidades autónomas y la unión europea y otros ministerios

saber cuáles son los propósitos de su departamento en la actual fase de elaboración y proceso de programación del plan estratégico de la pac

y alimentación cuál es en este momento o a día de hoy en la fase
del primer semestre la posición qué tenemos que aportar qué hemos hecho y qué podemos hacer muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio tal como comentaba usted ha hecho referencia a varios aspectos pero bueno me va a permitir que haga una revisión un poco de cómo va el proceso como usted decía

de transición y aún está sin completar en parte porque las instituciones europeas aún no han finalizado todos los aspectos que necesitan avanzar dentro de esos trílogos el próximo se va a celebrar entre los días veinticinco y veintisiete de mayo a la vez que se celebre el consejo de ministros de agricultura y pesca y es muy probable que ahí podamos tener ya un acuerdo final sobre la futura pac

presumiblemente se va a tratar en principio todo lo que es la arquitectura verde así como otros temas que ya han sido perfilados en diferentes propuestas pero que necesitan ser definidos

exacta como son repartos de ayudas por ejemplo en lo que supone el techo de ayuda que pueda tener cada explotación el pago redistributivo la ocm única todavía hay elementos que se encuentran sin definir completamente inciertos en cierta manera

en los últimos meses se han realizado numerosas reuniones numerosas revisiones avances en determinados aspectos que pueden ir configurando esa nueva pac y cuál ha sido nuestro proceso de participación en el proceso de participación de las comunidades autónomas se puso en marcha ya en dos mil veinte un proceso de participación como suele ser habitual

pac y en este momento todavía se encuentra abierto ese procedimiento

tanto la parte técnica como los directores y las directoras generales y otra que se aborda dentro de la conferencia sectorial por parte de los consejeros y consejeras con el propio

y el diez de diciembre de dos mil veinte se produjeron las dos últimas conferencias sectoriales de estas características a las que asistí como no podía ser de otra manera

con las diputaciones forales que también ostentan competencias en este caso y con las correspondientes asociaciones sectoriales en un ámbito de carácter más técnico están constituidos los grupos técnicos de alto nivel que se van reuniendo de forma permanente tanto en lo que se refiere al primer pilar como al segundo pilar van trabajando todo el tema del plan estratégico al que usted hacía referencia se van realizando diferentes tipos de reuniones suelen ser telemáticas en estos momentos a partir del año de septiembre del año dos mil veinte y nuestros técnicos nuestros directores y directoras van participando en todas y cada una de ellas señalar que en este caso

lo que hace referencia al segundo pilar es un poquito especial en el caso de euskadi dado que esa cofinanciación a la que usted hacía referencia en este caso

ahí tenemos un tratamiento un tanto especial y por tanto consideramos y creo que lo hemos conseguido dado que está ahí expuesto tal como usted decía que las comunidades autónomas tengamos dentro de ese plan estratégico que puede ser común y al cual no nos negamos se consideren las especificidades de cada comunidad autónoma y más en nuestro caso dado que cofinanciamos nosotros nuestros programas además se están produciendo reuniones bilaterales por parte del ministerio con todas y cada una de las comunidades autónomas nosotros tuvimos una reunión a finales del mes de abril donde expusimos nuestras posturas una vez más donde

de las comunidades autónomas que son diferentes y donde compartimos con el ministerio la necesidad de que se vayan cubriendo esos aspectos esperamos que el ministerio recoja las necesidades de todas las comunidades autónomas y nos haga una propuesta una propuesta por escrito configurando la pac que desde el estado español se va a hacer como propuesta

genuino cuáles son las regiones productivas el esquema de reparto de las ayudas directas la desaparición de los derechos y el proceso de convergencia el menú de ecoesquemas o la integración de las particularidades regionales en

todo esto en estos momentos todavía no existe no existe ese documento pero según información del ministerio tendremos una reunión

toda esta información esté ya disponible y podamos celebrar una reunión de conferencia sectorial y trabajemos ya sobre ese documento en el que cada uno ha expuesto sus

y que recoja los aspectos fundamentales que hemos ido exponiendo

y no conocemos exactamente cuáles van a ser esas reglas de juego y estamos centrados en trabajar en los diversos ámbitos que son de interés para nuestros agricultores

y nuestros ganaderos y ganaderas nuestro objetivo desde luego es no perder peso en todo ese aspecto relacionado con las ayudas con la parte económica y nuestra apuesta principal se la voy a comentar en este momento se recoge en las siguientes líneas

una regionalización como tenemos en estos momentos al uso basada en tipos de cultivo perjudica claramente al sector agrario vasco y lo que estamos pidiendo en estos momentos

a nuestro sector agrario y que sea considerado de forma específica más allá de lo que es vamos a decir la producción

en segundo lugar los pagos acoplados hemos solicitado que se consolide en la nueva pac el sistema de pagos acoplados hacia los subsectores que son más estratégicos en euskadi

y la remolacha que sean considerados de forma especial para que desde luego todo nuestro sector agrario y ganadero asociado a esos ámbitos tenga la consideración que ha tenido hasta estos momentos estos subsectores son muy dependientes de esos pagos acoplados y no podemos hacerlos desaparecer sin hacer desaparecer el sector por tanto necesitamos mantener el volumen de ayudas actual

en el reparto entre las comunidades autónomas siempre suelen quedar recursos

no tienen recursos para poderlas cofinanciar en nuestro caso pasa exactamente lo contrario dado que somos capaces de cofinanciar con nuestros propios recursos e incluso

como nos ha ocurrido en el año dos mil veinte somos capaces de establecer ayudas con recursos propios lo que solicitamos es que podamos ejecutar un mayor número de fondos y que exista un mecanismo que nos permita articular esos

que debemos ejecutar todos los fondos provenientes de europa y que no quede nada sin ejecutar sin duda además este incremento

donde el sector agrario el alimentario el forestal vasco desde luego tienen mucho que decir y se verían directamente beneficiados estamos

en nuestros casos solicitamos que se excluya a agricultores pasivos cuyo porcentaje de ingresos agrarios

defendemos un agricultor genuino lo llaman en europa pero una agricultor que desde luego sea profesional y estas

o no sean dedicados únicamente a complementar otro tipo de ayudas sino que estén dedicados al sector agrario y a quien realmente vive de ese sector una

la convergencia se produzca de forma gradual y que no sea algo abrupto el mantenimiento actual de los pagos acoplados tal como

la puesta en marcha de ayudas redistributivas en pequeñas explotaciones

un marco de ecoesquemas que posibilite el acceso a los mismos de cualquier agricultor genuino y con un sistema

y de manera general le decía que la región productiva sea flexible y que podamos aplicar todos estos conceptos de acuerdo con las necesidades

estos han sido básicamente y de forma muy resumida los planteamientos realizados al ministerio y que como le decía están siendo acordados también con las diputaciones forales quizá
en el segundo turno le pueda completar un poquito más todos estos aspectos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

muchas gracias presidenta sí gracias señora
tapia señora consejera por las explicaciones efectivamente usted nos ha dicho

su criterio y sus planteamientos pero está claro que tampoco conocen muy bien las líneas fundamentales del plan estratégico es decir la preocupación

la dimensión de la que estamos hablando está muy cerca y luego una negociación apretujada

puede ser complicada y por eso mismo eso es lo que me preocupa un poco ese retraso que puede llevar el gobierno de españa en relación con esta cuestión en ese sentido

cuando el treinta de noviembre cuando hicimos una pregunta a su señoría en relación con el acuerdo sobre la reforma de la política agraria común usted

y nos hacía una respuesta negativa negativa en el sentido de que no porque

que en las negociaciones llevadas a cabo de los distintos grupos tanto en la comisión como en el consejo en ningún momento

los valores que usted también ha puesto sobre la mesa tampoco compartimos la posición de posibilitar dentro de un plan estratégico estatal solo la regionalización del segundo pilar de la pac que era de lo que

en ese sentido no cumplía con el artículo noventa y uno del reglamento de bases de los planes estratégicos al no poder diseñarse y elaborarse conforme a las disposiciones constitucionales es un elemento preocupante vuelvo a hablar de que era una respuesta del treinta de noviembre

se han podido dar pero también nos hablaba en ese sentido de que

nos decía que no hasta la fecha pero hemos visto que hay por lo menos algunos contactos en relación con las conferencias sectoriales

en esta cuestión que es fundamental y que la hemos percibido y no solamente esta comunidad autónoma otras

parece que hay una disposición con el freno de mano echado en relación con las comunidades autónomas y que este liderazgo por parte del ministerio en estas cuestiones debería ceder un poco más de terreno de juego a las comunidades autónomas estamos hablando de cosas que son esencialmente competencia de las mismas y en ese sentido ahí están las claves

la cuestión a la que me refería antes del presupuesto menor de la pac para los próximos años

yo creo que es un elemento fundamental las organizaciones profesionales ya están sobre ese tema porque para llevar todas esas políticas implementadas que se van a exigir en la nueva pac los recursos si no son superiores va a ser muy complicado hacerlo pero está bien claro que el asunto es que hay que comprometer

en una mayor medida para el período veintiuno veintisiete siempre por encima de los del período catorce veinte hay que aplicar rigor y transparencia en el diseño del modelo de

no lo estamos viendo porque se podía estar sobre la mesa y las organizaciones profesionales también ven que hay cosas que no saben todavía por dónde van definir efectivamente como usted ha dicho el concepto de agricultor genuino

es decir es algo muy importante también en relación con la potenciación y el desarrollo de esta figura además hay cuestiones

al sector acceder a fondos del programa nacional de reconstrucción y resiliencia dentro del next generation de la unión europea y a aquellos fondos europeos

es decir y muchas otras cuestiones como ayudar al cooperativismo como uno de los mejores mecanismos para optimizar algunos costes de producción en algunas explotaciones impulsar la formación agraria alimentaria promover la investigación alimentaria garantizar la estabilidad de rentas de agricultores y ganaderos asegurar el futuro

es decir hay muchas cuestiones y algunas de esas va a haber que resolverlas

trasladadas a las comunidades autónomas a estas alturas esa es una cuestión que a mi grupo
le preocupa y que espero que se resuelva muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea señor barrio tal como decía en noviembre todavía no conocíamos cómo se iba a desarrollar todo ese

y en algunos aspectos hemos mejorado la situación pero no obstante tal como le decía todavía no disponemos de un documento que podamos

trabajar en esa primera quincena de junio y es por eso que le hemos solicitado al ministerio que antes de esa reunión evidentemente tengamos un documento en el que se recojan nuestras aspiraciones

que le he citado previamente que los hemos defendido junto con las comunidades

galicia asturias cantabria y euskadi hemos compartido unos ejes relevantes de actuación que han sido llevados al ministerio y además el ministerio los ha considerado positivamente bueno vamos a ver qué se recoge de todo lo que se nos va comentando en esas conversaciones y en esas áreas de trabajo en el documento final que insisto no lo tenemos todavía no es menos cierto y ahí

es verdad que desde la unión europea en la preparación

la nueva pac es decir se establece un plan estratégico único por estado es decir la europa de las regiones ha desaparecido y por tanto

debe existir un único plan estratégico por estado definido así lo que desde luego estamos trabajando en las comunidades autónomas en todo este tiempo

sea considerada dentro del plan estratégico único del plan estratégico estatal creo que es de especial relevancia porque ahí estamos perdiendo capacidad y nos ha hecho perder capacidad la propia unión europea en su planteamiento eso es así

los recursos que se han destinado es un debate finalizado los recursos destinados a la pac son los que son son menores como usted decía pero lo que aspiramos es que en base a definir bien figuras como la de agricultor genuino en base a definir bien las actuaciones y nuestra capacidad de ejecución de recursos

del periodo previo de programación seamos capaces de dotarnos en euskadi de como mínimo los mismos recursos que hemos tenido

que va a llegar hasta finales del dos mil veintidós por tanto todavía tenemos mucho que trabajar

posibilitar que tengamos un sector agrario y ganadero en euskadi desde luego que sea de actividad económica con un esquema justo y que posibilite su

y una vida digna a todas esas personas que están trabajando en el sector primario eso requiere de un esfuerzo importante en el momento de definir esta pac

de su actividad precisamente a ello y que no utilicemos estos recursos para otras actuaciones que son igual de relevantes pero que no se utilizan recursos de la pac para ello y finalmente señalarle me hablaba de los recursos

se dividen en dos ámbitos relevantes un ámbito que va a ser gestionado desde el propio ministerio de agricultura que no se va a regionalizar va a ser dirigido desde el propio

a regadíos y demás que no son excesivos pero los van a decidir ellos en función de una serie de proyectos que consideran prioritarios y en segundo lugar un

nuestras opciones nuestros proyectos y que confiamos en que puedan ser tenidos en cuenta por tanto son dos aspectos relevantes pero creo que esa estrategia que define europa de la granja a la mesa también la tenemos que considerar

alimentaria y en euskadi desde luego la consideramos la trabajamos y confiamos en poder
disponer de recursos next generation también en ese sentido eskerrik asko eskerrik asko

barrio jauna zurea da hitza sí muchas gracias

las consecuencias del proyecto epsilon euskadi proyecto que como todos

pagado básicamente con dinero público de las instituciones dinero que aún seguimos

este parlamento también analizó el fracaso empresarial aquel y sus responsabilidades en aquel momento y en una comisión

diversas informaciones también hemos visto que en relación con lo que afecta a aquel edificio

llamado marie curie del parque tecnológico de álava tras el fracaso de dos mil once del proyecto epsilon

de actuación prevista y aún queda en otro orden de cosas

pues una deuda pendiente que se prolongará supuestamente

hasta dos mil treinta y dos por los efectos del fracaso empresarial y por los avales

aquella manera por el parque tecnológico en aquel momento que

bastante increíble pero bueno ya se analizó también es decir que estamos pagando entre todos

que es posible que puedan ser más en relación con todas esas cuestiones

qué actuaciones piensa llevar a cabo su departamento en relación con el

epsilon euskadi en el parque tecnológico ahí se instala en un túnel de viento y a ustedes les toca tomar decisiones y nosotros queremos saberlas

conoce y por ello me lo pregunta que en el presupuesto del año dos mil veintiuno en el parque tecnológico de

para la redacción del proyecto y ejecución de obras para la habilitación y puesta en marcha del edificio marie curie para su transformación en un edificio multiempresa ello nos va a permitir que en lugar de tener un edificio

importante se pueda ejecutar unas obras de acondicionamiento que nos permitan

edificio pueda ser multiuso puedan utilizarlo una o más empresas y además en caso de que sea una empresa pueda también adquirir

un espacio algo menor y en función de las necesidades de crecimiento poder ir adquiriendo mayores espacios

podrá facilitar de alguna manera que proyectos que ya se han acercado en estos momentos

interesados en ese edificio pero que desde luego no lo necesitaban completo puedan albergar algunas de sus operaciones y ese es nuestro principal objetivo en este momento

ahí está el edificio después de lo ocurrido con el fracaso empresarial de epsilon

de una manera de esos diecinueve millónes aparte del mantenimiento de la limpieza de la seguridad

a hablar de las muestras de interés que se ha utilizado como un eufemismo desde

el interés de algunas empresas nunca se ha materializado nada efectivo nadie sabe nada y el edificio pierde su valor pierden sus instalaciones y ese

en el parque tecnológico de álava y en relación con esta infraestructura que nos hace además tener que ampliar capital tener que tener pérdidas todos los años

que es de una gravedad importante no sabemos si la reforma esta es un parche

ambiciosa y nosotros necesitamos un poco más de información sobre esta cuestión no ha sido tan grave lo que ha pasado se sigue arrastrando

ir más allá de los eufemismos para saber efectivamente dónde estamos en esa situación

despejar de verdad eskerrik asko barrio jauna tapia andrea zurea da hitza señor barrio
cuando hablamos de eufemismos cuando le hablo de muestras de interés son empresas que se han acercado al parque tecnológico para ver si podían instalarse en ese ámbito es verdad

qué ocurre que a pesar de ese interés el edificio tal como está es imposible comercializarlo de forma multiempresa por tanto lo que se ha elaborado desde el parque tecnológico es un plan

de tal manera que pueda realizarse por espacios tal como le he dicho que no tengan que ocupar la integridad del edificio y

operación hay que realizarla a través de ese proyecto que hemos puesto en marcha que aparece en presupuestos de tal manera que podamos albergar iniciativas que en este momento son imposibles

el aspecto exterior del edificio los materiales con los que se ha construido son atractivos y presentan la posibilidad de

esas empresas necesitamos realizar una labor de acondicionamiento que no obstante también le tengo que señalar que está condicionada a que pueda existir algún interés especial

en ese espacio por tanto trabajamos con los dos ámbitos de actuación si existe alguna empresa que quiere ocupar lo todo por cierto tendrá la prioridad absoluta si no existe esa empresa continuamos con el trabajo para comercializarlo por partes y acondicionarlo para que así pueda ser utilizado eso nos va a permitir desde luego que

paliadas y también se habla de trabajarlo de diferentes maneras tal como se hace en cualquiera de los otros parques tecnológicos en euskadi

pueda ser a través del alquiler de espacios e incluso pueda ser con un alquiler con opción de compra trabajamos en todos los ámbitos y también le tengo que señalar que en este momento el dinamismo y la actividad que se observa en el parque tecnológico de miñano nos hacen ser optimistas en cuanto a la comercialización de este ámbito del edificio

que reúne una serie de complejidades que requieren el máximo esfuerzo por parte de lo público

tenemos un parque tecnológico en la zona que se hizo bueno en el patio trasero de petronor que se ha gastado se artificializado

estaba artificializada mientras tenemos suelos industriales en desuso

en los accesos y en las carreteras cuando ese dinero se podía haber invertido en otra cuestión si el objetivo no hubiera sido

en la puerta trasera el hidrógeno bien muy bien pero cuidado con el hidrógeno no vaya a ser que primero estemos ante una nueva burbuja y hay muchos indicadores que indican que se están generando más proyectos de lo que la demanda real es capaz de absorber y luego cuidado con el modelo de hidrógeno que queramos desarrollar porque como usted bien sabe no todo el hidrógeno

de negocio con un revestimiento seudoverde a cuenta del hidrógeno hay que apoyar a las empresas en sus procesos de transformación pero tampoco podemos permitir que se les regalé el dinero

está para acompañar y si vienen inversiones fuertes por parte de lo público esas inversiones tienen que venir acompañadas también por una participación en la propiedad de los proyectos

de la transición justa que en principio es un concepto destinado a acompañar cierres de centrales térmicas nucleares minería quizás jurídicamente no encaje al cien por ciento

pero creemos que la filosofía sí que encaja es decir una actividad muy fuerte altamente productora de carbono que se va a reconvertir necesita un acompañamiento para que

y también las zonas en las que se producen esas transformaciones no se vean disminuidas en cuanto a sus posibilidades socioeconómicas

sí que les pedimos que estén junto a las empresas pero les pedimos también que tengan un liderazgo

las estrategias de transición justa existen los convenios de transición justa existen las posibilidades de aplicar de forma análoga a este caso

y de los fondos que existen para ello están ahí y eso es un poco lo que les venimos a pedir no se limiten a hacer lo que han venido haciendo hasta ahora

tengan apuesta por la zona y tengan capacidad de estar en los proyectos no solo

siempre bajo la guía del empleo de la calidad del empleo y de la transición hacia proyectos verdes eskerrik asko eskerrik asko

hayamos interiorizado el concepto de que el gobierno debe a las empresas que no la sustituimos que las acompañamos me alegro de verdad de que haya interiorizado ese concepto nos ha costado una legislatura pero bueno parece que lo hemos conseguido

trabajando intensamente de la mano e incluso por delante hablamos

importante importante a día de hoy desde luego si lo tuviéramos construido estaría lleno estaría lleno porque no solamente hablamos de industrias asociadas al oil gas y su futuro sino que hablamos también

y de otro tipo de energías es un parque tecnológico asociado al ámbito energético y desde luego creemos que tenemos mucho potencial hablando de hidrógeno porque hay que hablar de él no es la panacea pero también hay que hablar y le he dicho desde el principio hidrógeno verde y tenemos que hablar

pioneros en ponerlo en marcha no hemos esperado a que se aprobara la ley ayer sino que desde luego este proyecto lleva ya tiempo gestándose hablamos de

que participar en ibil hace mucho tiempo cuando se pusieron en marcha las unidades de recarga de vehículo eléctrico con participación del gobierno en el accionariado

no es que nos lo pida hoy y lo tengamos que hacer mañana es que ya lo hemos hecho antes lo hemos hecho con repsol y lo hemos hecho con petronor y tenemos que continuar trabajando con una estrategia propia

renovables hidrógeno verde y desde luego tratar de trabajar por la eficiencia energética esa es la hoja de ruta que tenemos en la que vamos a acompañar con participación y con subvención a todas las empresas que lo necesiten eskerrik asko

renove planari buruz gil jauna zurea da hitza gracias señora presidenta buenos días señora consejera

recientemente nos ha alegrado ver en la prensa el anuncio de que su gobierno a través del ente vasco de la energía ha presentado un nuevo plan renove para automoción

como usted sabe nuestro grupo presentó en este parlamento el día diez de febrero

hace muy poco tiempo una propuesta no de ley proponiendo la creación de un plan renove exactamente igual

no olvidando la renovación del parque actual de vehículos con tecnología diesel y gasolina y esta propuesta bienintencionada

resulta que recibió el voto negativo de su partido y del soe sin ningún intento de acuerdo

los concesionarios están en una situación muy crítica nuestros ciudadanos como saben necesitan ayuda sin demora y ahora vemos que lo que hace tres meses resultaba inaceptable ustedes lo intentan hacer pasar ahora como un gran logro bueno hemos visto en la prensa algunos detalles del nuevo plan pero nos gustaría oír de la propia voz de la señora consejera

que ha anunciado su gobierno eskerrik asko gil jauna erantzuteko tapia andrea

zurea da hitza señora consejera supongo que ese objetivo ecológico sería el mismo hace tres meses que ahora no veo por qué ese retraso lo justifica
de todas formas en el plan renove de dos mil veinte ocurrió algo curioso y es que cientos de personas

no pudieron recibir las ayudas pese a cumplir los requisitos porque como ustedes saben se agotaron los fondos en septiembre de dos mil veinte desde el ente vasco de energía se hacían llamamientos para que los usuarios siguieran inscribiéndose en el plan renove por si volvía a dotar de más fondos

que cumpliendo los requisitos no tuvieron subvención y por qué animaron a apuntarse a un listado si su intención no fue en ningún momento ampliar dicho plan

es por tanto para nuestro gusto un presupuesto insuficiente

el presupuesto se va a agotar rápido y aún así dotan al programa de la mitad de fondos que el año pasado

es sacarse la foto ahora una vez que rechazó nuestra propuesta en este mismo parlamento

cuando se vio obligado a ampliar los fondos del plan es decir en vez de hacerlo de una vez directamente lo dividen en dos porque así su objetivo es la foto y no ayudan realmente

es ayudar a la gente que lo necesita a tener coches más seguros y más nuevos y ese objetivo repito

que ahora por otra parte es un plan que va a ayudar a las personas de más bajos ingresos

necesario pero efectivamente nos parece que se están utilizando fondos públicos para ponernos medallas de partido muchas gracias eskerrik asko

el plan que gestionamos desde el ente vasco de la energía lleva ya cinco años funcionando por lo tanto podemos decir que ya hemos quitado bastantes vehículos antiguos de la carretera y por tanto lo hemos dotado con cinco millónes de euros porque consideramos que quitar otros dos mil quinientos vehículos antiguos de la carretera es un objetivo importante y no olvidemos que existe en el plan moves segundo es decir el del año pasado que no ha agotado sus recursos

dotado con muchísimos más recursos este año y con más ayudas y que por tanto nos va a ayudar a descarbonizar y a poner vehículos eléctricos en la carretera lo dotamos de

a partir del uno de junio va a estar en vigor y por supuesto todos aquellos que cumplan los requisitos y que acrediten que han cumplido los requisitos hasta que se determinen los recursos podrán disponer

de estas ayudas para comprar vehículos nuevos pero insisto no es el único programa

a cumplir esos requisitos por tanto cuando ponemos en marcha un programa de estas características no solemos hacerlo de una manera a la ligera

relevante es más el pasado año una vez finalizado este programa analizamos lo que ocurrió con los cuatro programas de ayudas previos y observamos que se había cumplido bastante bien el objetivo de quitar vehículos antiguos de la carretera

vamos a considerar que puede ser además el último de estas características dado que ya ha cumplido en muchos de esos objetivos e insisto si estamos trabajando para

nuestros vehículos electrificar las carreteras y si de verdad nos creemos que esa ley que se aprobó ayer y otra ley que traeremos al parlamento vasco también tiene que ir en esa dirección bueno pues tenemos que trabajar todos para que eso sea una realidad y desde luego no olvidarnos de un elemento muy importante está bien comprar

por tanto tenemos que trabajar en todas y cada una de las líneas no solo en esta eskerrik asko

presidente andrea osasun sailburua bueno este nuevo hecho demuestra desastrosa gestión de la campaña de vacunación que está realizando el gobierno vasco y

una clara improvisación la viceconsejería de

de álava también de bizkaia y de gipuzkoa que se iba a proceder a la vacunación de los letrados que prestan servicios de urgencias en la comisaría

estos abogados sean vacunados cuál es la sorpresa que cuarenta y ocho horas después una vez elaborados los listados

señala que ya no se va a proceder a la vacunación de este colectivo sin duda hay un cambio de criterio que no tiene justificación aparente y el propio decano del ilustre colegio de abogados de álava redacta una carta

el colegio de abogados de bizkaia mostrando su sorpresa incredulidad

la verdad es que estas cosas señora consejera no se entienden y sobre todo porque causan un desconcierto en este caso a un colectivo concreto y a la población en general y más

que parece ser que el proceso de vacunación no se lo está tomando lo serio que se lo tiene que tomar por eso le preguntamos cuál es la razón

de esta dimensión en apenas cuarenta y ocho horas eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

la razón es una y única un aviso explícito del ministerio de sanidad para que no se proceda a esa vacunación eskerrik asko

ustedes son los que están apoyando al gobierno de pedro sánchez en madrid

en la comisión correspondiente interterritorial en la comisión de salud pública en otros órganos en donde se establecen los criterios de la vacunación es decir ustedes tendrán información entiendo que ustedes tendrán que tener algún tipo de información o desde luego cuando una comunicación dirigida a un colectivo importante para proceder a su vacunación tendrán las certezas de que los criterios

de pedro sánchez y de podemos en madrid digo que eso les permitirá tener algún tipo de

no sucedan en cualquier caso pues igual ustedes actuaron con demasiada rapidez y tenían que haber esperado a que ese criterio estuviera perfectamente establecido pero al final lo que yo le quiero poner de manifiesto más allá de quién tenga la culpa que puede ser incluso compartida digo porque bueno pues los criterios son unos pero viendo también cómo actúa el gobierno

en algunas cuestiones una prudencia cuando hay criterios tan cambiantes y no lanzar cartas dirigidas a colectivos

a los colegios correspondientes pero más allá esto evidencia también pues una muestra más de un modo de actuar en todo este proceso de vacunación

fueron que se avisaban a colectivos cuando otros la vacunación de colectivos anteriores no estaba finalizado fue la web

se llama a las personas mayores a vacunar a las diez de la noche son muchísimas cuestiones señora consejera que están poniendo de manifiesto claramente que no se está liderando y no se está haciendo por parte de este gobierno vasco lo que se tiene que hacer para que esta gestión

mire señora garrido usted siga mezclando unas cosas con otras y ahí un batiburrillo para que nadie se entere parece encima que tiene argumentos pero no es así usted sabe bien a estas alturas

a la ponencia de las vacunas y luego se aprueba en la comisión de salud pública y así es cómo luego todas las comunidades autónomas seguimos

esas líneas para adecuarlas a nuestras comunidades

veces hemos tenido que adecuar hasta el momento esa estrategia siete veces por qué pues también lo sabe muy bien porque yo le he contado todo en la comisión de salud pública semanalmente mismamente séptima actualización de la estrategia de vacunas

incorporó al proceso de vacunación a los colectivos llamados esenciales fue porque la indicación que era una indicación científica

era para personas por debajo de los cincuenta y cinco años y ese es el motivo por el cual esas personas menores de cincuenta y cinco

los otros grupos en personas mayores que solo pueden vacunarse en aquel momento con pfizer y moderna aún seguían su proceso de vacunación lo hemos contado varias veces pero como

como ocurrió con otros colectivos esto es con el sanitario o el de personal de riesgo

lo más ajustada posible de los esenciales destinatarios de esas vacunas

y con la vacunación de los miembros de cuerpos de seguridad y de prisiones menores de cincuenta y cinco años desde el departamento de igualdad

a los abogados de los turnos de oficio como a los dos colectivos por qué por su presencia en comisarías y dependencias a las que han de acudir para atender a sus clientes frecuentemente y debieran por lo tanto incorporarse

también nos lo pidieron sí los colegios de abogados y el propio tribunal superior de justicia del país vasco así lo consideramos lo preparamos

de sanidad se enteró según la secretaría de estado por los medios de comunicación parece que alguien lo contó porque nosotros no hemos contado nada simplemente entraban dentro de este grupo y envió una instrucción

una orden directa del ministerio eskarrik asko eskerrik asko

señores miembros del gobierno que quedan aquí a estas horas señorías bien la interpelación que he planteado que hemos planteado desde nuestro grupo a la señora beatriz artolazabal tiene que ver con una serie también de iniciativas y de interpelaciones

relativos a lo que está siendo la transferencia o mejor dicho el traspaso de los medios materiales y humanos personales

la transferencia de prisiones he presentado distintas iniciativas en este parlamento simplemente para conocer una cosa para que se hiciera la luz para que tuviéramos luz y taquígrafos para saber de qué manera se estaba negociando este traspaso de competencias o de medios

y sobre todo en qué condiciones iban a llegar sin embargo el discurso del gobierno más que centrarlo en eso ha ido siempre por

un modelo un modelo de ejecución penitenciaria distinto del que está aplicando en este caso el gobierno central distinto del que se aplica

que he considerado importante presentar hoy esta interpelación para darle la oportunidad a la señora consejera que nos explique ya que parece que prisiones después de

para que nos explique para que nos ilustre para que nos dé luz sobre cuál va a ser este modelo

un poco en antecedentes en primer lugar tres cifras que son las tres que han trascendido

que han trascendido a través de la prensa no será por la falta de preguntas de interpelaciones etcétera

que he planteado yo ante esta cámara de hecho aprovecho para recordarle señora consejera que tiene usted pendiente cumplir con una resolución de esta cámara que establecía que una vez que estuviera cerrado el acuerdo

toda la información relativa a cómo había sido ese acuerdo

es distinta de la iniciativa un poco que yo presenté pero bueno los partidos del gobierno finalmente la aprobaron así con el apoyo de otro grupo las tres cifras que decía

yo creo en mi opinión y es bastante fácil comprobarlo encierra alguna trampa algún engaño y sobre todo

bien yo creo que aquí vamos a tener va a tener la administración un problema y es que

tercer grado que quiere decir desarrollar pues la gran mayoría del espacio vital y sobre todo del día fuera de las prisiones es verdad que está ya la mitad pero mil trescientos son

y cuando hay otros que están fuera no quiere decir solamente que haya otras personas que hayan vivido toda su vida en euskadi y que es que están fuera en otra cárcel

sino que pueden ser también que son personas que consta que tienen arraigo que consta que tienen arraigo en euskadi hay bastantes según

que es el sistema informático penitenciario es el que recoge precisamente estas estadísticas pues hombre

que se calcula que tengan arraigo en lo que es euskadi y que debemos saber cómo va a quedar por eso era el interés de plantear estas preguntas hace tiempo buscando también una política de prevención y de ver un poco en qué iba a quedar la cosa puede haber un grupo sustancial de personas presas que al final acaben siendo asignadas a las cárceles de euskadi

setecientos son aproximadamente se dice los funcionarios que van a pasar a depender del gobierno vasco en unas primeras declaraciones que salieron como siempre en prensa no en este parlamento el gobierno habló de que bueno que había alrededor de mil funcionarios etcétera y tal ya le dije yo

estos son los funcionarios qué es lo que nos ha preocupado qué les ha preocupado al gobierno de los funcionarios pues mire los funcionarios en todo este proceso han estado también bastante al margen es cierto que desde que ha nombrado a usted a este nuevo alto cargo

pues han estado visitando las cárceles el otro día estuvo aquí en la de basauri previamente había estado en otra está bien que haga una serie de visitas a las prisiones pero hombre yo creo que habría que haber contado con los funcionarios que por cierto son los que saben cómo se va ejecutando la política penitenciaria y que van a pasar a depender de su departamento a lo largo del proceso los sindicatos pues la verdad es que tampoco tampoco

informados y mire que es que a los sindicatos en cada proceso legislativo

en este proceso precisamente no de esos funcionarios qué lo que ha interesado pues mire fundamentalmente interesaron dos cosas según me consta

y luego el tema del conocimiento del euskera hombre si luego

a mí me parece estupendo que la administración efectivamente fomente que se pueda utilizar y que las personas podamos comunicarnos en el lenguaje que sea en el idioma que sea de nuestra elección

que todos los funcionarios individualmente hablen euskera para poder cumplir con este derecho que pueden tener las personas

la tercera cifra setenta setenta millónes parece que es la cantidad en la que se ha calculado finalmente cuál va a ser

lo que es la competencia en prisiones y se ha aplicado el famoso criterio del seis coma veinticuatro por ciento

si el criterio es este qué pasa si ahora de repente nos viene una cantidad superior

con este presupuesto o sea el presupuesto no ha estado basado en la cantidad de centros penitenciarios

yo creo que esto merece también una explicación por parte de su departamento yo insisto en todo este proceso y

interpelación la consejera registró un documento registró un documento

en el parlamento al que efectivamente ya finalmente hemos podido tener acceso los distintos grupos y bueno

en el que esencialmente se dice los principios básicos del modelo penitenciario vasco van a ser el principio de la dignidad de la persona hombre solo faltaba

qué pasa hasta ahora no se está respetando la dignidad humana segundo principio reducción del uso de la prisión es que más de la mitad

eso no es reducción del uso de la prisión ya tercer principio principio de resocialización en el ámbito comunitario hay actividades y hay un montón de situaciones y de proyectos que permiten que las personas se vayan reinsertado las personas que están presas incorporación de la perspectiva de género pues también también según me consta igual que la perspectiva restaurativa

empezó con la competencia de prisiones completa menos en el caso del país vasco

en manos del gobierno central y luego la tercera el principio de integración de las políticas públicas pues lo mismo una coordinación entre administraciones que ya venía existiendo

yo insisto que después de haber leído esta documentación espero

presentación pública de lo que va a ser este modelo pero bueno yo creo que hoy tenemos aquí la oportunidad y le agradezco además que haya venido a comparecer hoy y a explicarnos porque insisto a mí todo esto

existe una prisa por parte del gobierno vasco para apuntarse un tanto político en un cierto momento de debilidad

y en segundo lugar yo creo que aquí están ustedes compitiendo con la bancada de enfrente porque aquí el acuerdo que además

no está con nosotros pero el señor egibar lo ha dicho aquí el acuerdo de dos a la semana

cuál es la finalidad de todo esto cuál es ese modelo que se nos dice al final todo esto en lugar de establecer traernos informes traernos estudios mire vamos a ejercer esta competencia o la aplicación de la política penitenciaria de esta manera no en vano el otro día dijo usted hombre

pues sería prevaricar no pero yo el temor que tengo es que aquí esto se pueda convertir en una situación en la que queramos establecer una política

distinta de los criterios que son comunes

señorías por eso señora consejera hoy aquí le hago esta interpelación y le pido simplemente que nos arroje luz le pido luz cuáles son los propósitos de su gobierno

la llamada competencia en prisiones incluyendo la implementación en euskadi de este nuevo modelo penitenciario que recientemente ha enviado usted en un documento a este parlamento muchas gracias

más a la ciudadanía que estará informada de primera mano y no por los mensajes tendenciosos que salen de los entornos de su coalición gracias a usted vamos a poder volver a trasladar nuestra alegría en primer lugar por la llegada tras cuatro décadas después de una simbólica competencia establecida en el estatuto de gernika leyendo su justificación

sin embargo parece que no presta la misma atención cuando esta consejera expuso hace quince días y ya también hace meses

y no se preocupe volveré a repetírselo las veces que haga falta no obstante antes de comenzar con la exposición debo rectificar una cuestión que plantea en su pregunta

y esta consejera como usted ha dicho ya ha solicitado comparecer a petición propia ante el parlamento para poder explicar el acuerdo del traspaso y las bases para la implantación del modelo penitenciario en euskadi tan pronto como se ha materializado señor

en qué se iba a materializar y se ha remitido al parlamento y a los grupos parlamentarios el documento de bases al día siguiente de dicho acuerdo se firma el lunes

yo pido solicitud y traslado el informe sin esperar siquiera a la fecha de entrada en vigor de ese mismo acuerdo que como usted sabe y es jurista que para que sea efectiva

sin perjuicio de que la gestión de lo referente al trabajo penitenciario se difiere hasta el uno de enero del dos mil veintidós

reconozca que son ganas a veces de hacer ruido por lo menos yo así lo entiendo de soliviantar a la opinión pública

qué pretenden en realidad lanzando continuas insidias

condicionar tengo que cuestionar también otro punto de la justificación de su interpelación a qué se refiere cuando dice que en mi departamento y cito textualmente

le aclaro que el departamento de igualdad justicia y políticas sociales hasta ahora solo ha incorporado a una persona para asesorarnos en todo lo relacionado con instituciones penitenciarias

una persona que se incorpora para ayudarnos a desarrollar con sus conocimientos profesionales el modelo penitenciario vasco que usted denosta y critica sin como ha reconocido

entenderá que la asunción de esta competencia va a requerir de la formación de un equipo humano que ya antes del uno de octubre prepare la transición a la nueva situación

se trata del inicio del embrión de un modelo que necesita desarrollo y mucho trabajo además de muchas dosis de profesionalidad compromiso e ilusión hemos tomado como punto de partida las cincuenta y nueve resoluciones que el parlamento vasco aprobó en dos mil diecinueve y la propuesta técnica elaborada por un equipo multidisciplinar de expertos

sábado retomamos públicamente un proceso de escucha y contraste con los diferentes agentes relacionados con las prisiones personal entidades dirección y víctimas por supuesto

ahora ya voy a tener y ya voy a tener la oportunidad de conocerlas porque ya tengo las citas concertadas que no contraprogramo le anuncio que a este encuentro asistirán los dos directores de zaballa y basauri y la directora de martutene que junto al resto de nuestro equipo y de representantes de otros departamentos del gobierno vasco

y que trabajan en el día a día con el colectivo de personas presas

reitero que hablamos de personas de recuperarles para la sociedad a través de un trabajo socioeducativo y centrado en sus carencias y activando iniciativas que les devuelvan a la sociedad

con un trabajo individualizado que trate de aportarles itinerarios con nuevas oportunidades para su integración y quiero subrayarle que apostamos por un modelo que piensa respetuosamente en las víctimas señor gordillo porque no puede ser de otra manera

las víctimas son y serán el centro de nuestra política de convivencia y de derechos humanos porque la deuda contraída con las víctimas

unas víctimas que nos han dado un ejemplo de resiliencia generosidad de mirada al futuro sin odio y sin venganza

víctimas y política penitenciaria no son términos ni antagónicos ni confrontados

desde el total respeto a la preservación de la dignidad y los derechos de las víctimas izan ere ezin da bestela izan

no se entienda que salvaguardar los derechos de las personas presas supone un agravio a las víctimas y tampoco olvidamos por supuesto que quienes entre muros lo están por una sentencia judicial o por la comisión de un delito en sus manos estará acogerse y aprovechar las herramientas sociales que ponemos a su alcance estoy convencida que con nuestro modelo conseguiremos una sociedad más segura y más justa aplicaremos una perspectiva de género con especial atención a la doble condena

vigilaremos la salud de los encarcelados y encarceladas con especial atención a la salud mental a las adicciones

este modelo supone individualizar la ejecución de penas y medidas en medio abierto y también impulsar programas específicos de tratamiento individualizado dentro de la prisión y garantizamos los actuales derechos y condiciones laborales del funcionariado y personal laboral que en la actualidad desarrolla su trabajo en las cárceles vascas

quiero hacerles llegar también mi reconocimiento a su difícil y necesario trabajo por el que vivieron amenazados durante los años más duros del terrorismo estos

un trabajo necesariamente interinstitucional una labor necesariamente

desde salud a función pública desde educación a seguridad desde emakunde a lanbide

ustedes parecen centrar toda su atención en cuatro decenas de encarcelados en mi departamento

personas que están en la cárcel porque han cometido un delito y que nos esforzaremos y deberán esforzarse ellos también para que regresen a la sociedad reinsertados y no excarcelados una vez cumplidas sus condenas las palabras tienen mucho significado señor gordillo nos critican también usted lo ha dicho

y otro número más importante de origen vasco que podría pedir el traslado a euskadi provocando así una saturación de nuestras cárceles

actualmente las prisiones en euskadi están al cincuenta por ciento de su capacidad y para solicitar o aceptar traslados de cárceles españolas a vascas y viceversa ya existen y están establecidos mecanismos interinstitucionales en concreto el real decreto unolaurehun eta hogeita hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita lau

los novecientos sesenta presos y presas que no tienen delitos terroristas no parece que estén en sus prioridades y parece una obviedad pero quiero también aclararle una cosa

sin arbitrariedades con bases objetivas y criterios técnicos y con la última palabra del órgano judicial competente

de derechos humanos eskerrik asko artolazabal andrea

que el modelo de este gobierno es el modelo de los derechos humanos el modelo penitenciario de este gobierno es el modelo de los derechos humanos

me acusa usted de hacer ruido pero bueno yo creo que no hay nada más sonoro que el clamoroso el silencio en muchas de las cuestiones que les he ido planteando si analiza bien las preguntas

a lo mejor no usted directamente a su compañera en su momento la señora garamendi porque cuando estaba todavía la competencia en trámite de negociación tampoco estaba muy claro si las interpelaciones en este sentido había que planteárselas al señor erkoreka

pero bueno yo ahí lo que he pedido en todo momento ha sido que nos informe que informe a esta cámara es lo que he pedido en todo momento y hombre lo que nos han contado hoy que por cierto ya se desliza o ya lo han filtrado previamente a la prensa tampoco es nada nuevo

cuáles son esas condiciones hombre tiempo han tenido dice no yo en cuanto he podido he venido hombre si no les presento yo las interpelaciones es que ya

yo creo que esto es un tema suficientemente serio pero como

es un tema que hay que analizar con cuidado para ver cuál es la forma también más eficiente

cuáles van a ser las implicaciones de la coordinación en fin yo le vuelvo a insistir hombre los nombramientos que ha hecho me dice que no ha nombrado a nadie

con el que tengo la mejor de las relaciones personales me parece un jurista muy competente a ver qué tal le va en este cargo no es lo mismo ser profesor de universidad que parlamentario tampoco es lo mismo ser juez que miembro del gobierno a ver qué tal le va en el cargo cuando lo tengan que criticar siempre en los parámetros de lo que es la política pero hombre no me diga que no ha hecho nombramientos dice no es que las cárceles

no he ido a las cárceles porque todavía no son nuestras el sentido patrimonial

me va a decir que el señor tapia no ha visitado ninguna cárcel estos días no

si esto se sabe esto se sabe y las reuniones con el tercer sector pero es que el tercer sector ya viene colaborando también

lo que se da cada vez que se busquen asociaciones específicas del tercer sector que acaben haciendo la política de reinserción social que ya la vienen haciendo los funcionarios de prisiones es que

lo que se observa usted me dice que yo soy sesgado y tal yo lo que observo en su plan precisamente es una carga sesgada importantísima de un desmerecimiento de la labor que ejercen los funcionarios de prisiones

y hacen una extraordinaria labor de reinserción social y más de la mitad de las personas presas de euskadi están en tercer grado

de cómo son las progresiones y regresiones de grado de todas las cárceles de españa se dará cuenta de que las de las cárceles vascas son ya precisamente ya lo eran o venían siendo las que

mayor número de progresiones analicen esos datos y se darán cuenta es decir no voy a hacer como me suelen hacer sus compañeros

pero hombre yo creo que es mal forma de comenzar si ya comenzamos estableciendo que no es que hasta ahora se ha hecho mal o todo ese ha hecho mal en el tema de las prisiones no lo dicen así pero implícitamente se deduce

el modelo que vamos a establecer ahora es de colaboración con el tercer sector no colabora ahora el tercer sector

eso es lo que necesitamos creo yo y que es conveniente que usted aclare en esta cámara cuál va a ser el modelo específico analizaremos el documento que nos ha enviado y todavía tenemos pendiente que nos envíen más detalles y sobre todo

sobre supuestas cuestiones que quedan todavía ahí competenciales pendientes

por supuesto que hemos analizado con cuidado los gastos de personal las coordinaciones hombre como no podía ser de otra forma señor y lo de la carga sesgada jo yo para carga sesgada son las declaraciones que ustedes

le damos prisiones al país vasco para que los presos etarras sean recompensados por la gran labor que han realizado matando en españa la transferencia es el primer paso para indultar a los presos de eta las cárceles no pueden ser boutiques

sánchez pacta con el pnv la excarcelación súbita de los presos

resarcir a las víctimas y colaborar con la justicia esto sí que es sesgado señor y además irresponsable y otra serie de calificativos

parece que ustedes además saben más del modelo penitenciario vasco de lo que dicen por todas las declaraciones que han venido haciendo

nadie ha expresado es como si un tribunal dictara sentencia antes de haberse cometido el delito y todo

buscar titulares grandilocuentes arengando a la ciudadanía con insinuaciones burdas facilonas y sobre todo muy lejos de la realidad no es ser responsable al contrario es ser muy irresponsable y le ruego que a nadie

no venga a darnos lecciones de moralidad de buen hacer o de defensa de las víctimas de eta en empatía y en cercanía no me van a ganar

y condena a eta tampoco me van a ganar ustedes no pueden ni deben utilizar el dolor de miles de personas en beneficio propio y no cometan por favor

y no me cuestione mi respeto a quienes han vivido en primera persona el azote terrorista entre los que incluyo con toda mi empatía a sus compañeros del partido popular

cuando azuzan a la ciudadanía con acusaciones falsas hablan de resort una cárcel es un lugar de privación de libertad donde las personas internas están vigiladas veinticuatro horas y duermen en celdas que se cierran por la noche

hablan de indulto disculpe pero que lo que se nos ha transferido ha sido la gestión la organización y el funcionamiento de las cárceles la elaboración o las decisiones de la política penitenciaria permanecen garantizadas en última instancia por la autoridad judicial como usted bien lo sabe y la potestad de indultar no está entre las competencias de este gobierno

me temo que no han entendido o no han querido entender nada bases para la implantación del modelo penitenciario en euskadi en euskadi

esto es una carrera de fondo que necesitará de varias legislaturas hasta alcanzar la sociedad madura que deseamos llegaremos a nuestra meta a través de una gestión honesta sincera y leal basada en la resocialización y en la justicia restaurativa que también será beneficiosa para las víctimas podría concluir diciéndole que si no quieren participar en este proceso hágase a un lado

sin lanzarnos manipulaciones ni mentiras pero no es mi estilo

y les insisto que tienen una oportunidad para poder participar en la creación de este modelo que es un modelo de trabajo en el que vamos a tener en cuenta las necesidades de las personas que se encuentran

para darles una nueva oportunidad y no no intenten tergiversar la acción que este gobierno quiere llevar adelante por tanto

tener sus aportaciones y poder llevar adelante una oportunidad que desde luego

eskerrik asko mahaiburu andrea la verdad es que ha costado décadas ha costado décadas tener la competencia

esto es importante tenemos la competencia pero ahora la cuestión es

de prisiones vasco cuál va a ser cómo lo queremos diseñar entre quienes cuál es nuestra apuesta

cuáles son las principales líneas en las que se está trabajando se está basando el gobierno vasco en el diseño del modelo penitenciario para euskadi y yo

hecho los deberes y se ha presentado un modelo y que es un modelo además que tiene unas líneas estratégicas básicas que

nos parecen correctas se habla de enfoque restaurativo resocializador

saludamos este enfoque de todas maneras
sería cómo tienen la intención de hacer esta transición cómo pasamos del modelo que tenemos al que queremos tener eskerrik asko eskerrik asko

de otra forma y además contando con la colaboración de todos los agentes y de todas aquellas personas que tienen algo que decir en lo que es el tratamiento de estas personas

pero además lo queremos hacer entre todos y entre todas el pasado miércoles coincidimos en la comisión en la que presentamos el plan de justicia juvenil y yo además

todos los grupos que estábamos en la cámara todos sin exclusión estábamos

que es una de las bases de nuestro modelo de justicia juvenil compartimos preocupaciones compartimos también soluciones incluso y anhelos de mejora continua después de que hace veinticinco años recibimos aquella competencia es una carrera de fondo porque en el año noventa y cinco

del sistema vasco de justicia juvenil y transcurridos veinticinco años bueno pues estamos viendo los frutos de aquel trabajo verdad el uno de octubre comienza otra carrera de fondo otra maratón y para ello

pero también de la experiencia que después de dos décadas de trabajo en justicia juvenil tenemos

tenemos posibilidades de construir nuestro propio modelo dentro de los márgenes establecidos por la legislación y por los reglamentos penitenciarios desde la asunción como no podía ser de otra forma

del ámbito judicial pero un primer dato relevante es que mientras que en el gobierno español las instituciones penitenciarias siguen siendo gestionadas por el ministerio de interior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

la asunción de esa competencia de instituciones penitenciarias y eso además se une a la incorporación a nuestro equipo de jaime tapia juez que además no solamente es un gran jurista sino que también es una persona con unos valores humanistas muy profundos por tanto hemos hablado del modelo penitenciario vasco porque pretendemos conferir a aquellas competencias unas sensibilidades que nos permita

en un primer momento en esta primera fase nos vamos a concentrar en lo penitenciario

y no querríamos tampoco generar expectativas exageradas a corto plazo insisto

y que ahora no le voy a detallar las cien medidas que vienen recogidas en el documento que remití a la cámara

que este trabajo es fruto de muchas reuniones con el tercer sector social

con los responsables de los centros penitenciarios también me he reunido con los representantes de los funcionarios de prisiones porque son una parte fundamental de cara a poder mejorar si cabe un trabajo que ya se venía realizando de forma adecuada en las cárceles vascas esta es una competencia muy sensible como ustedes todos saben que afecta a un millar de personas

y también a las víctimas y creemos que estamos ante una oportunidad y que la cercanía va a mejorar la gestión apenas unos trazos muy breves para decirle cuáles serían nuestros objetivos en primer lugar trazaremos la mejor situación de las personas privadas de libertad mediante el reforzamiento de los

y luego una progresiva mejora en lo que es la responsabilización de las personas privadas de libertad y yo

artolazabal andrea gorrotxategi andrea zurea da hitza bueno sí yo le agradezco la respuesta la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo y yo supongo que tendremos

en cualquier caso es verdad que las intenciones son buenas pero para que las intenciones no queden en papel mojado luego hay que hacer cosas y claro hay muchas preguntas que todavía quedan por responder

qué tipo de formación se va a ofrecer a las personas que trabajan en las cárceles con qué

también tenemos que responder tenemos que saber si se van a mejorar las instalaciones para poder llevar a cabo este nuevo modelo que se pretende con qué agentes sociales ha comentado que ha contado con que se ha reunido con agentes sociales bueno cuáles son esos agentes sociales y cuál va a ser el procedimiento en el cual se les va

más allá de las líneas generales de la estrategia y bueno

que sería bueno que pudiéramos trabajar juntas en todo esto

y otras muchas preguntas que surgen eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea